hemos debatido en innumerables ocasiones temas relacionados con el empleo la formación la inclusión social y también

al hablar de las tasas de desempleo hemos insistido y coincidido

fríos números se hallan personas con realidades diversas y necesidades muy distintas siempre hemos manifestado la preocupación por las nefastas consecuencias que la falta de empleo acarrea para las personas y los colectivos más vulnerables poniendo siempre también a su vez en valor el sistema vasco de protección social que evita

entre estos colectivos señalaremos a los y las jóvenes mayores desempleados y desempleadas personas con discapacidad personas en riesgo de exclusión nos gustaría que nos aclarara qué otros colectivos además de los que hemos mencionado

en el departamento y qué medidas concretas relacionadas con el empleo la formación y la inclusión social de estos colectivos tiene previsto continuar desarrollando lanbide lo que queremos saber es la cuantía que se destina a cada uno de estos colectivos en las distintas partidas generales de formación inclusión social y empleo gestionadas por lanbide porque los presupuestos como no podía ser de otra manera nos dan

pero no entran en detalle en exponer las medidas concretas que se dedican en cada programa o y servicio para cada uno de estos colectivos

a cada uno de los grupos beraz hori da gure gaurko galdera lanbidek

tenemos otros programas el programa de empleo con un monto de doscientos veintiséis millónes de euros el veintiuno por ciento del presupuesto del departamento el de formación con otros ciento once millónes de euros el diez por ciento del presupuesto

se destinan ochocientos veintidós millónes de euros a la financiación de lanbide pero sobre todo detrás de estos números

hay personas hay personas que no lo pasan bien

que buscan empleo o están empleadas y lanbide les presta servicios para mejorar su calidad y para que se mantengan estamos hablando de colectivos especialmente vulnerables estamos hablando de personas de larga duración de personas con discapacidad de personas en riesgo de exclusión de personas inmigrantes si concretamos desde lanbide destinamos a estos colectivos las siguientes partidas a estos colectivos vulnerables acciones de formación para el empleo a través de la financiación de recursos formativas para la inserción laboral más de cuarenta y seis millónes que

programas de fomentos de empleo mediante bonificaciones y ayudas para centros especiales de empleo y empresas de inserción y colaboración también en la financiación de planes locales de empleos

y se destinan a personas desempleadas doscientos millónes de euros a personas con discapacidad treinta y ocho millónes de euros a jóvenes

sozialistak izan ginen eaj eta alderdi popularrarekin batera anunciar en los medios propios de la radiotelevisión pública

presos políticos vascos no es cumplir con los compromisos asumidos por la misma radiotelevisión ni por su gobierno ni por usted mismo señor lehendakari

y en el desarrollo del programa las personas que aparecen en él son víctimas del mismo sí señor lehendakari

en el documental ventanas al interior se nos presenta a cinco personas que han sido merecedoras de la condena por parte de la justicia pero no se hace mención expresa a las consecuencias que tuvo la actividad terrorista que ejercieron o apoyaron emitir un programa de estas características no ayuda precisamente a preservar la memoria y dignidad de las víctimas euskadi tiene un reto para la convivencia admitir que no hubo ninguna razón para matar a nadie que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos y desde las instituciones desde el servicio público de radiotelevisión

en promover ese principio para que nunca más pueda repetirse lo que hemos sufrido en euskadi por eso le pregunto si considera el lehendakari que el servicio de radiotelevisión pública vasca
responde al compromiso institucional y mayoritario de esta cámara de deslegitimación del terrorismo eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

me pregunta si considero que el servicio público de radiotelevisión pública vasca responde al compromiso institucional y mayoritario de esta cámara de deslegitimación del terrorismo y le digo sí sin ninguna duda el servicio público de e i te be responde al compromiso institucional y mayoritario de esta cámara

cumple con este compromiso no parece proporcionado ponerlo en duda por la valoración que pueda suscitar la emisión de un documental al que usted hace referencia señor unzalu

en aquel momento además se instó su ilegalización

para la misma por enaltecimiento o legitimación del terrorismo en consecuencia el documental se ha emitido libremente en salas de cine y centros de cultura

no comparto en absoluto su mirada acrítica con el pasado ahora bien respetar el pluralismo significa estar dispuesto a escuchar opiniones que no nos gustan la pluralidad de opiniones de nuestra sociedad debe tener un cauce en e i te be siempre que estas no incurran en el enaltecimiento ni la legitimación del terrorismo

creo que tenemos diferentes puntos de vista usted y los socialistas al respecto voy a empezar diciéndole que usted tiene certificado el compromiso expreso de los socialistas

que padecieron las víctimas una afirmación de los valores democráticos

y una pedagogía de deslegitimación radical de cualquier agresión que olvide que los derechos humanos muy especialmente el derecho a la vida son indisponibles y esta frase es suya

y eso precisamente no estaba en el documental que emitió e i te be y no vale apelar a que no son responsables de los contenidos como usted lo ha hecho si usted exige proactividad

para deslegitimar el terrorismo debe hacer lo mismo con etb

pero fíjese usted la libertad de expresión cómo se trata en el medio público de radiotelevisión

por un lado este programa ventanas al interior se emite en horario de máxima audiencia y a continuación se emite otro reconciliación

las víctimas reales que han sufrido en euskadi los años de terrorismo

en etb señor lehendakari desde nuestro punto de vista se trata con más dignidad a los victimarios que a las víctimas del terrorismo y me estoy remitiendo a pruebas concretas programas que no se emiten porque los veta la dirección de etb o programas como este que son relegados posteriores a ventanas al interior

queremos sobre todo éticas señor lehendakari con principios irrenunciables
por hoy no se da le instamos señor lehendakari a que tome cartas en el asunto usted está legitimado para ello y creo que es su responsabilidad muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

e i te be señor unzalu ha querido recordar que ha condenada sin ambages el uso de la violencia

de que la emisión de este documental no presupone en ningún caso compartir su tesis o contenidos la propia e i te be ha reconocido que su emisión precisaba un contexto de situación y explicación su emisión en este sentido

ha admitido que cometió un error al utilizar la expresión presos políticos en su nota de prensa un error que subsanó de inmediato dando las explicaciones oportunas

ha querido reafirmar su compromiso con la sensibilización social por la deslegitimación del terrorismo su compromiso con la difusión y promoción de los valores cívicos

y creo que hoy conviene recordar que e i te be defendió este compromiso en momentos muy duros y que fue incluso objeto directo

todas las instituciones clave de nuestro país están clara y firmemente comprometidas frente a la violencia y en favor de la convivencia también e i te be el gobierno así lo promueve

demanda así lo promueve así lo seguirá promoviendo y así lo practica por lo tanto no es justo ni positivo ni proporcionado ponerlo en duda eskerrik asko

que formulamos esta pregunta al ejecutivo pero se han cometido irregularidades en varios procesos de selección no lo dice el partido popular lo han constatado los tribunales de justicia y uno de ellos hay que decir que bastante significativo por afectar al exconsejero de sanidad el señor inclán

confirma la sentencia del juzgado contencioso administrativo número seis de bilbao y anula la concesión de la plaza de jefe de sección de medicina interna del hospital de cruces

el proceso selectivo la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco señala claramente que la decisión fue la adjudicación

de publicidad y que había defectos en la composición del tribunal y en los criterios de baremación ha habido algún otro caso significativo como fue el de la plaza de jefe de servicio de dermatología del hospital universitario de álava la sentencia en este caso hablaba claramente también de abuso de poder no se nombró a la persona que había obtenido mayor puntuación dirigimos una pregunta en su momento similar al señor lehendakari hace unos meses que contestó el señor

nos conteste el señor lehendakari en el caso concreto la reformulamos porque esta sentencia ya es firme

para vulnerar y en este caso de una forma tan evidente la legalidad vigente

señora garrido supongo que entenderá por qué le voy a contestar yo pero lo primero que me gustaría decirle es que su desconocimiento de lo que son los procesos de selección y previsión

mire este gobierno es responsable y establece los procedimientos de selección

usted sabe que en el caso concreto por el que se ha interesado o por los que se ha interesado corresponden a un ente público de derecho privado por lo tanto en este proceso este gobierno

ez hautaketaren oinarrizko printzipioak evidentemente tiene usted todo el derecho

resulta evidente que el único interés es desprestigiar al gobierno por el hecho de que uno de los participantes del proceso de selección al que ha hecho referencia sea un exconsejero de sanidad pero mire a día de hoy es un profesional

en activo con todos sus derechos a participar en los procesos de selección que los entes públicos o administraciones públicas convoquen solo faltaría mire las gerencias de las organizaciones de servicios del ente público osakidetza

que la ley les atribuye tienen la facultad de convocar losprocesos de selección para la cobertura de los puestos de jefatura por cierto puestos de concurso

hablamos de concursos por esto dentro de las atribuciones de los y las gerentes

y son los responsables de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su desarrollo

los nombramientos el baremo etcétera los tribunales de selección en osakidetza además independientes están sujetos a las bases de las convocatorias y a la ley y sus decisiones son vinculantes para la administración

oportunas o ante los tribunales de justicia y no tenga dudas

y aceptar y respetar esto implica que cuando hay un fallo judicial definitivo se acata se cumple y se ejecuta como se ha hecho señora garrido

pero si usted ha leído las sentencias imagino que las habrá

en relación a la actuación irregular a la provisión de estas plazas en este caso por concurso

creo que es muy significativo el caso del concurso que estamos hablando porque se le nombró al señor inclán qué casualidad del gobierno del partido nacionalista vasco qué quiere que le diga que

la atención y ha sido anulado ese nombramiento y por lo tanto el señor inclán ha tenido que dejar su puesto yo no dudo de la profesionalidad del señor inclán pero está claro de que se han cometido irregularidades y no se han cumplido los principios inherentes a un proceso de selección en este caso

al señor lehendakari a ver si a la tercera va la vencida y me responde él pero espero que no haya tercera vez y que por lo tanto ya con esta pregunta

no veamos en las páginas de los diarios nuevos casos como estos y que luego los tengamos que ver

detrás de los cuales se esconden intereses partidistas

que no les correspondía apartando a las personas que realmente les correspondía no además el caso del señor inclán ha habido otros casos también muy significativos en los que este gobierno

claros de enchufismo en donde se han antepuesto y el caso del señor inclán es evidente
el amiguismo y los nombramientos a dedo a la profesionalidad en un servicio público como es osakidetza eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

señora garrido yo respondo muy a gusto en ámbitos que creo que son de mi competencia pero mire

el tribunal superior de justicia no ha dicho en ningún momento que este gobierno incumple los principios básicos en los procesos de selección no lo ha dicho

a ningún miembro del tribunal ni al propio tribunal tampoco ha pedido responsabilidades a la administración ni siquiera le ha condenado a costas lo que ha dicho es que se retrotraigan las actuaciones al momento de redacción de las bases

en el tribunal calificador por cierto que tampoco había en el otro tribunal que ha mencionado usted porque es la primera vez en doce años y ha habido más que piden un miembro del ivap desde el punto de vista judicial ahora bien

en buena medida generado por ustedes no es precisamente ni facilitador ni garantista por la multiplicidad de normas existente a la que hay que añadir la singularidad que el régimen estatutario

que su partido político estaría el día siguiente en el parlamento de cataluña para mostrar su apoyo a mas y al pueblo catalán en el proceso

es decir el partido nacionalista vasco es decir su partido político mostraba así su apoyo a un proceso ilegal contrario a la constitución española

vaya por delante que me parece un ejercicio vergonzoso de hipocresía y cobardía políticas se apoya en cataluña un proceso ilegal

al menos de momento esto ya ciertamente me parece un ejercicio de hipocresía y de cobardía lo habitual por otro lado en el partido nacionalista vasco pero

a las preguntas que yo le quería plantear apoya usted como apoya su propio partido político ese proceso de ruptura ilegal

y a quién apoyan ustedes concretamente a los corruptos del tres por ciento

embargadas a los que han fracturado la sociedad catalana a los que han conseguido que cataluña sea rebajada a bono basura a los que vulneran

apoya exactamente el partido nacionalista vasco y a quién apoya usted por decirlo claramente señor lehendakari apoya usted a los golpistas catalanes

señor maneiro por más que lo intente no voy a caer en sus provocaciones

y que también de esto podríamos hablar mucho en relación a lo que es el respeto también a las decisiones en el parlamento vasco pero voy a centrarme en que el origen de esta situación lo encontramos como mínimo por decirlo en fechas hace cinco años el tribunal constitucional laminó un estatuto de autonomía que había sido aprobado por el parlamento de cataluña el congreso y el senado y que había sido ratificado en referéndum por el pueblo catalán nada de golpes señor maneiro durante cinco años las instituciones

que les ha sido negada de forma sistemática por el gobierno español el día veintisiete de septiembre se celebraron en cataluña unas elecciones democráticas

el día nueve de noviembre pasado el parlamento constituido de forma legal y democrática

que obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los representantes elegidos esta declaración vuelve a solicitar la apertura de una negociación para dar respuesta

la respuesta ha sido judicial pero la cuestión política sigue planteada y sigue sin respuesta y la respuesta judicial ha sido la de suspender esa declaración

la cercanía y atención a la voz del pueblo respeto el proceso de cataluña defiendo la vía del acuerdo y del pacto y apelo en este sentido también a las palabras del presidente mas

sabe lehendakari que es lo que upyd reclama que en cataluña y en cualquier parte del país

que se respete y se cumpla la constitución española eso es lo que reclamamos

porque la mejor forma de defender la democracia es acatar las resoluciones judiciales y la propia legalidad vigente y usted no ha sido capaz de decir esto y por lo tanto lo que viene es a defender una resolución ilegal y un proceso y por lo tanto un golpe de estado que es lo que se ha cometido recientemente en cataluña qué es lo que proponemos por lo tanto nosotros además de que se cumpla y se haga cumplir la ley evidentemente activar la vía penal activar la vía penal y además activar también el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española que por cierto no tiene como objetivo suspender la autonomía en cataluña sino

los derechos de todos esto es lo que pretende hacer el artículo ciento cincuenta y cinco y por lo tanto reclamamos que también se active el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española pero lo que me parece ciertamente vergonzoso es que nuestro lehendakari apoye un proceso que es claramente

ciertamente lo que a nosotros nos parece absolutamente vergonzoso el partido nacionalista vasco es decir su partido político dijo que apoyaba ese proceso ilegal

catalanes y usted ha vuelto a hacer lo mismo usted lo que debería hacer es defender la democracia y defender la legalidad vigente y censurar

en cataluña que es un proceso ilegal de ruptura de la propia sociedad catalana ciertamente triste por lo tanto señor lehendakari que tengamos

de defender la democracia la legalidad vigente y el estado de derecho ciertamente lamentable eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro es evidente que su concepto de democracia y el mío no son iguales usted ha hecho referencia a

defiende partiendo de unos prejuicios calificando un proceso ilegal sin tener en cuenta lo que yo en la primera intervención había dicho que yo reclamo un diálogo político para solucionar un problema político desde el respeto a lo que son las instituciones legítimamente y democráticamente constituidas

yo defiendo la legalidad para proporcionar cauces de solución a las demandas de la ciudadanía no como un corsé para prohibir las ideas señor maneiro

por las vías democráticas he reiterado la necesidad de abordar la construcción del futuro político desde el diálogo y el acuerdo desde la política y los valores de la democracia solucionar un problema comienza por reconocerlo y el reino de españa debe reconocer su realidad plurinacional no es momento de frentes habría sido positivo y yo así lo habría deseado que en las reuniones que se han mantenido en moncloa en zarzuela en el consejo de estado

se hubiera planteado una reflexión a fondo y de carácter político y reclamo que en el futuro se pueda abordar esta situación para dar y para ofrecer viabilidad y cauce de solución a la crisis del modelo territorial de estado

que ahora mismo no existe en esta cámara un especial interés por debatir y por decidir sobre la cuestión del derecho a decidir

el comodín de la ponencia de autogobierno se ha acabado porque incumpliendo la propia promesa electoral del grupo político proponente

esta legislatura no habrá ni propuesta política ni texto articulado ni consulta no habrá nada de todo esto de este modo tenemos que decir

lugar para poder hacerlo que la ponencia se ha convertido en la coartada perfecta para no debatir para no acordar para no decidir y para no consultar y no nos resignamos no nos resignamos y queremos

acordar queremos decidir y queremos consultar y queremos utilizar los instrumentos que brinda esta institución para poder hacerlo y por eso

el derecho a debatir en esta cámara sobre este tipo de cuestiones porque por desgracia también se está negando la posibilidad a que podamos debatir sobre este tipo de cuestiones en esta cámara

el concierto económico o sobre la lth pero también se tiene que debatir sobre este tipo de cuestiones y no se puede seguir utilizando la ponencia de autogobierno como comodín para no hacerlo y si no somos capaces de hacer todo esto lo que a nosotros y a nosotras nos corresponde por lo menos seamos capaces de apoyar de acompañar y de ayudar a quien sí está demostrando capacidad para hacerlo es decir

y a las instituciones catalanas queremos nos gustaría tener un gobierno vasco que no se distinga por su lealtad al reino de españa sino por su compromiso con su pueblo y los derechos que democráticamente

queremos un gobierno en ese sentido y un parlamento que tome medidas concretas que acuerde medidas concretas para apoyar acompañar y ayudar al parlament y al govern catalán en este proceso

ese gobierno y por supuesto esta cámara van a contar con todo el apoyo y toda la disposición necesaria por parte de eh bildu

por lo menos que sea para apoyar ayudar y acompañar al proceso catalán porque entendemos que el proceso catalán es en gran medida también el proceso vasco es el proceso de un pueblo que está luchando por su libertad dentro de un estado y ese estado es el mismo que oprime a nuestro pueblo el cual también está luchando

handik bere inbestidura saioan esan zuen la subordinación tiene un costo

tiene un precio hay que saber elegir entre asumir el costo de la subordinación

esta propuesta de declaración es consecuencia de un proceso que se inició hace como he dicho antes en la intervención anterior como mínimo

esta situación ha sido fruto de la cerrazón del gobierno español

y en lugar de cumplir la palabra dada y respetar este acuerdo parlamentario plural se procedió a su cepillado se hizo además ostentación pública del mismo a pesar de ello el presidente mas y las instituciones catalanas siguieron adelante y sometieron al estatut a referendo popular

el partido popular organizó una recogida de firmas para presentar el recurso de inconstitucionalidad y se hizo nuevamente una gran ostentación pública

declarados inconstitucionales una vez que había sido ratificado ya en referéndum por la sociedad catalana el partido popular volvió a exhibir ostentosamente

yo creo que lo que vivimos hoy es consecuencia de años de desencuentro y tensionamiento de las relaciones políticas e institucionales que es el resultado y

la desorientación y la incertidumbre la falta de diálogo político ha sido una constante de esta legislatura en españa y en euskadi también lo conocemos bien de forma reiterada hemos pedido al presidente rajoy encauzar desde el acuerdo institucional y político la agenda económica

y el autogobierno vasco la puerta sigue cerrada y somos conscientes de que solo

con una nueva actitud de los partidos políticos y de un nuevo gobierno usted habla

para veintiuno cargos públicos institucionales

ustedes siempre reclaman a los demás y le recuerdo que este parlamento ha conocido la inhabilitación

inhabilitados por defender la autonomía de este parlamento la autonomía de este parlamento en favor de la defensa también de la personalidad de su grupo parlamentario no recuerdo por su parte adhesiones ni reconocimientos señor arraiz todo lo contrario

las conozco perfectamente usted es consciente de mi posición porque es pública

además de con la exvicepresidenta y exconsellers me he reunido con el señor mas en tres ocasiones le he trasladado mi respaldo con cercanía y sinceramente me entristece que en estas circunstancias ustedes no lo hagan a la persona del señor mas ustedes o

reconocemos y respetamos el camino emprendido por cataluña al igual que artur mas reconoce y respeta el camino emprendido por euskadi así lo ha expresado desde el inicio de mi relación

la necesidad de abrir cauces políticos para dar respuesta a las aspiraciones legítimas y mayoritarias en cataluña y en euskadi he trasladado este ofrecimiento
a las instancias del estado y en ese camino voy a seguir eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

agian entzuteko aukerarik ez da egon eta errepikatuko dut si la libertad tiene un precio muy alto en nuestra opinión

zaudetenik ezta gutxiago ere quiero recordar también

aquí ya nos lo dieron hace diez años cuando ni siquiera se admitió a trámite

ni siquiera se admitió a trámite ese portazo ese agravio y ya está dado aquí y sin embargo parece que seguimos contemporizando en torno a las posturas de insumisión que aquí cada cual puede decir y

seguramente en esta bancada habrá más insumisos que en otras

no tengo ningún problema en reconocer el paso dado por el presidente del parlamento en aquella época y el resto de la mesa no tengo ningún problema en reconocerlo aunque creo que cumplieron con su función

y se apoya constantemente este gobierno se apoya en otro tipo de cuestiones para tratar de justificarlo cuando en realidad creo que lo importante es que falta esa voluntad política para hacerlo nosotros y nosotras no representamos aquí a ningún partido político ni a ningún grupo

con todos y con todos muy buena relación y bastante coincidencia política en torno al momento

de hecho también quiero recordar que la delegación de eh bildu acudió a ese pleno invitada por

y nuestra relación allí es con todas las fuerzas políticas de cataluña sobre todo con las que están implicadas

en este proceso para llevarlo hasta el final de hecho lo que nosotros y nosotras reivindicamos es que

y antes he señalado y creo que es lo importante hay que reivindicar el diálogo y la necesidad de negociación y acuerdo con el estado sí hay que seguir reivindicándolo por supuesto que sí que si no hay diálogo por parte del estado que no lo hay y no lo va haber

hay que seguir inmóvil pues nosotros y nosotras décimos que no que hay que seguir moviéndose que hay que seguir dando pasos en la vía vasca hacia la soberanía en cataluña es lo que han hecho durante todo este tiempo han recibido noes de continuo

para sortear esa dificultad y seguir con el proceso adelante por qué porque había voluntad política por todas las partes

aquí tenemos una mayoría parlamentaria que solo es necesario activarla para que desde esta institución ese proceso también se pueda poner en marcha

y a día de hoy no está puesta en marcha no está activada esa mayoría parlamentaria porque hay una parte que no lo quiere

depositado el debate en un instrumento en una ponencia para precisamente que no se haga ese debate

para que no se decida y para que no se consulte aun y todo reiteramos nuestra disposición al diálogo al acuerdo a la decisión

ditugunak le he dicho y le vuelvo a decir respeto las posiciones y decisiones del parlamento de cataluña propuse además trabajar conjuntamente señor arraiz si me quiere escuchar

antigua propuse a mas trabajar conjuntamente por un nuevo modelo de estado

euskadi ha optado por el suyo en virtud de su propia historia de su propia realidad y de sus propias circunstancias y cada uno el señor mas y yo creemos en nuestra vía y respetamos la del otro y así lo ha expresado también

proponemos un acuerdo entre los partidos políticos vascos y un pacto con el estado ustedes han estado muchos años en un callejón sin salida en lugar

ofrecer al conjunto de las formaciones políticas y particularmente al partido nacionalista vasco y al lehendakari de nuevos frentes que ustedes mismos

usted mismo ha tenido bien conceder son tiempos de encontrar

nadie falta y nadie sobra en la ponencia de autogobierno

el cauce para avanzar en el autogobierno y seguir construyendo de forma progresiva euskadi en una europa más fuerte y abierta tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto aquí

y la bilateralidad efectiva con el estado desde el acuerdo somos parte de un pueblo que partiendo de los territorios forales

nuestros derechos históricos reconocidos y amparados pueden dar de si tanto cuando pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr acuerdos institucionales primero aquí

adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas son nuestras aspiraciones políticas

también tenemos el deber de encauzarlas con inteligencia y respeto a la pluralidad y la convivencia y seguir nosotros ejerciendo

de gobierno y servicio público también en el día a día esa es mi voluntad como lehendakari eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

por hacer un poquito de memoria señor lehendakari en el año dos mil once el gobierno de españa tiene que tomar unas medidas drásticas para poner remedio a la desastrosa situación económica y financiera en la que se hallaba

del entramado institucional del país existía ese riesgo ese miedo

de negro que iban a venir y que iban a hacer cosas y entre esas medidas

tuvieron que tomar las recogidas en el real decreto ley veinte barra dos mil once

a los funcionarios a los empleados del sector público del país se les retuvo la paga extra temporalmente no fue

indefinida fue una retención temporal se dejaron de hacer las aportaciones de las administraciones públicas a las entidades de previsión social voluntaria a muchos

se les obligó a trabajar más días porque había que aumentar la productividad fueron medidas valientes valientes y desagradables en un momento muy delicado que al partido popular le costaron

lo sabemos todos y hubo que hacerlo y hubo que hacerlo y hubo que

tenía el honor de dirigir a un grupo de funcionarios y ellos lo trasladaban esas medidas sentaron muy mal porque fueron muy duras y muy desagradables y siempre pagaban los mismos y siempre pagaban los funcionarios pero estoicamente lo aguantaron no se notó en absoluto

las medidas siguieron trabajando sin hacer ruido como siempre algunos sí

a la plaza de la provincia incluidos cargos públicos del partido nacionalista vasco que se ponían a gritar detrás de la pancarta pero luego aquí con las mismas medidas no venían a protestar era una cosa

la cumplieron y se beneficiaron de alguna manera de aquellas medidas con los importes ahorros que en los sucesivos presupuestos tuvieron al no tener que hacer esas aportaciones a las entidades de previsión social de los funcionarios en el dos mil trece en el dos mil catorce en el dos mil quince tampoco

por ley luego también les supuso un importante ahorro en el dos mil trece en el momento de aprobar la ley

presumió que había enmendado esa ley de los presupuestos y que conseguían que se permitiera por fin reanudar las aportaciones pero el gobierno vasco no lo hizo otras administraciones sí el otro día me decía el señor erkoreka que había muchas administraciones que no lo hacían

que dentro del país vasco las tres diputaciones forales sí lo hicieron y pudieron hacerlo porque habían hecho los deberes cumplían los requisitos que establecía la ley

nos ha preocupado mucho que la semana pasada cuando los consejeros comparecían en las diferentes comisiones para explicar el contenido de los presupuestos y fueron interrogados por ello

durante el ejercicio dos mil dieciséis y por eso yo le quiero preguntar hoy le quiero interpelar y estoy seguro de que me va a responder satisfactoriamente

para cuándo es esa previsión de reanudar esos derechos restaurar todos esos derechos de las decenas de miles de empleados del sector público

es un hecho que de un tiempo a esta parte la normativa básica del estado que afecta a la función pública responde más al propósito de garantizar la estabilidad presupuestaria y contener el gasto público que al objetivo

de establecer el común denominador normativo que

hay un dato que yo creo que pone clarísimamente de manifiesto que esto que digo es así

de estas características normas básicas del estado que afectan a la función pública invoca como título competencial no

el que reconoce al estado la competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios sino el recogido en el punto trece de ese mismo precepto el que habla de las bases y la coordinación de la planificación en general de la actividad económica por lo tanto las normas más importantes de la función pública las que

el contexto en el que se ha llevado a cabo la gestión de los recursos humanos por parte de las administraciones en los últimos tiempos medidas como las congelaciones salariales

las tasas de reposición todas estas no tienen un fundamento

sino sencillamente un fundamento estrictamente financiero son los compromisos el régimen de gobernanza económica de las administraciones públicas

es un hecho también que el modelo de gobernanza económica este modelo de gobernanza económica instituido en el estado español para las administraciones públicas que está básicamente recogido en el artículo ciento treinta y cinco de la constitución

y en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera subordina radicalmente las gestiones las políticas de personal de las administraciones públicas las subordina totalmente

todo lo que puede hacer cualquier administración pública en el ámbito de su competencia en materia de gestión de personal todo queda subordinado como cualquier otra política al cumplimiento de esos objetivos de estabilidad presupuestaria inexorables vinculados con el límite del déficit

a partir de un momento determinado en fin es un hecho creo yo también que el partido al que usted pertenece ha sido un actor fundamental

de ambos esquemas tanto en la definición de las normas básicas del estado que se inspiran en los objetivos de estabilidad económica como también

económica que limita todas las políticas de personal de las administraciones públicas

a nivel estatal el gran valedor de estos planteamientos políticos ha sido

toda la regulación que ha establecido en el ámbito de la administración pública estaba radicalmente subordinada a los criterios y objetivos fijados en el terreno de la hacienda y aquí en euskadi el gran valedor ha sido el grupo parlamentario popular al que usted pertenece porque desde hace ya muchos años

habla de la contención del gasto y de una regla fundamental de no subordinar el gasto corriente a los compromisos de deuda no se endeuden jamán no se endeuden jamás para financiar gastos corrientes este es un mensaje una reivindicación habitual tradicional

dice usted que el año dos mil doce por imperativo de la ley se

social voluntaria de los empleados públicos es verdad pero no es toda la verdad es cierto que la primera medida que adoptó el gobierno de rajoy en cuanto se hizo cargo de la responsabilidad de gobernar la primera medida fue ese real decreto ley al que ha hecho usted referencia veinte barra dos mil once de treinta de diciembre

a entidades de previsión social voluntaria por parte de las administraciones públicas una medida por cierto que perjudicaba a otras administraciones públicas no al gobierno central

este es el modo en el que ha venido gestionando el gobierno central las medidas de carácter básico en el ámbito de la función pública en función de sus propios intereses y su propia realidad

le decía que era verdad pero le decía que no era toda la verdad porque no es menos cierto que con carácter previo a esa fecha el gobierno vasco

sometido a restricciones las aportaciones a las entidades de previsión social voluntaria el año dos mil diez el año dos mil once

ya se habían ajustado las aportaciones a las entidades de previsión social voluntaria

sino porque había unos objetivos de estabilidad presupuestaria inexorablemente establecidos a través de ese mecanismo de bonanza económica impuesto para las administraciones públicas que lo imponía

el año dos mil doce no lo hizo el trece no lo ha hecho el catorce y tampoco lo ha hecho el quince pero no lo ha hecho porque esta prohibición

si usted se mira repasa las leyes de presupuestos generales del estado de todos estos últimos años podrá comprobar que existe una prohibición para hacer esas aportaciones taxativa es cierto que a partir del año dos mil catorce se modula esa prohibición como consecuencia de una enmienda que presenta el grupo parlamentario vasco en el congreso de los diputados una enmienda que es aceptada solo en parte porque la condición que impone el gobierno central

que se podrán hacer aportaciones siempre que esas aportaciones no supongan un incremento de la masa salarial y en el caso del gobierno vasco esas aportaciones suponían siempre

por tanto hacer aportaciones a las epsv durante los años catorce quince trece

son salario diferido conceptualmente son salarios que se presupuestan en el capítulo

que ha seguido muy de cerca todas las medidas que se adoptaban por parte de las administraciones públicas en este ámbito y

no pocos recursos contra las medidas adoptadas por las diferentes administraciones en contra de estas previsiones incluso aquí en euskadi no es el momento de hablar de los recursos que ha interpuesto pero son muchos claro usted da por supuesto que

no sé por qué lo da la ley de presupuestos generales del estado para el año dos mil dieciséis en su artículo diecinueve apartado tercero reproduce literalmente

siguen sin poder hacer aportaciones a entidades de previsión social voluntaria de empleados públicos

el caso del gobierno vasco usted me está diciendo cuándo van hacer esa aportaciones hombre el año dos mil dieciséis

que acaban de aprobar las cortes generales con el apoyo básico del grupo parlamentario popular esa norma está en vigor está en vigor a partir del uno

hacer aportaciones que supongan un incremento de la masa salarial

sí pero son administraciones que pueden acogerse a esa excepción porque o tenían esas cantidades consignadas en el capítulo primero y por tanto hacer las aportaciones no suponían un incremento de la masa salarial

aportaciones pudieran hacerse efectivas sin que el

hoy por hoy lo que usted me está pidiendo es que incumpla objetivamente

que acaba de ser aprobado por las cortes generales si esto me lo dijera eh bildu

pero comprenda mi sorpresa cuando veo que el que me plantea precisamente es usted cuando

siempre y cuando se levante esta prohibición que todavía se mantiene por parte del gobierno central

conforme a lo regulado ya en la ley de presupuestos que está aprobada publicada

gracias presidenta señor lehendakari me ha decepcionado usted

los funcionarios eran una preocupación para usted y que me iba a responder directamente porque es algo que afecta a todos los departamentos y que entiendo que es una decisión que como responsable de todo el gobierno ha tomado usted y de la que se hacía responsable y que por lo tanto me iba a responder pero no ha sido así

parlamentario y ha venido aquí y nos ha echado la culpa a los del partido popular le ha echado la culpa al gobierno de españa

el de san sebastián el de bilbao no han incumplido la ley y han reanudado las aportaciones yo creo que la causa es más bien otra

por qué no está la previsión en los presupuestos qué me va a decir es que no me lo permite la ley o es que no tengo interés en estos funcionarios es que no quiero pagarles

abonar en este ejercicio o la previsión para el ejercicio que viene el setenta y cinco por ciento de lo que falta en los presupuesto del dos mil dieciséis lo tienen lo consignan y lo abonan

podrían hacerlo no se lo prohíbe ninguna ley pero usted me está diciendo que las aportaciones a las entidades de previsión social voluntaria

pero que la ley no se lo permite ninguna de las instituciones a las que me he referido que yo sepa ha recibido ninguna

han ajustado el gasto han dispuesto de ese dinero de las mismas fuentes que es que el presupuesto de esas administraciones sale de los mismos bolsillos de todos los ciudadanos vascos yo no sé como me decía usted el otro día sinceramente ni me preocupa mucho qué va a ocurrir en la comunidad autónoma de canarias con estos temas a mí me da igual a mí me preocupa la mía

yo lo que les pido a ustedes es que sigan siendo punteros y si la ley lo autoriza porque no lo prohíbe taxativamente lo que dice es en qué casos se puede hacer

ese dinero y restauren los derechos de los trabajadores públicos yo creo que ustedes dirigen la empresa más importante del país vasco

yo creo que en toda empresa el departamento de recursos humanos tiene un peso muy fuerte porque es fundamental tener contentos a los trabajadores y ustedes

sobre todo cuando ven cómo otros trabajadores del sector público de euskadi dependientes de otras administraciones ven cómo esas administraciones sí han hecho los deberes sí están reanudando esas prestaciones de la misma manera que han abonado

de manera extra la paga extra retenida en el dos mil doce

a solucionar pero como veo que no es así pues me veré obligado a presentar una moción

eskerrik asko legebiltzarburu andrea yo comprendo perfectamente su posición señor ruiz de arbulo la comprendo perfectamente y el sentido de esta iniciativa y de otras que están presentando

en las últimas semanas comprendo porque después de cuatro años aplicando inexorablemente a la función pública la ortodoxia presupuestaria que impusieron ustedes

después de cuatro año recibiendo críticas por ello por ser los principales responsables ahora a dos meses de las elecciones

con la reconvención severa de la comisión europea diciéndoles que ustedes están rompiendo quebrando la ortodoxia que usted mismos han preconizado pero

parece que permite excusar ese tipo de ortodoxias que han venido defendiendo hasta ahora

que una vez que se han liberado de esa presión pues quieran demostrar ante todo el mundo que

creo yo que usted ha hecho un cálculo equivocado me ha hablado del debate que tuvo lugar en esta cámara hace unas semanas en relación con las pagas extras pero el tratamiento jurídico de las pagas extras y de las aportaciones es completamente diferente

sigue estableciendo esta prohibición usted me dice presupueste mire le voy a explicar cómo ha operado esto de la masa salarial de la prohibición inexorable puesta por la ley de presupuestos generales del estado desde el año dos mil catorce en relación con las aportaciones

el año dos mil doce se liquidó el presupuesto sin ninguna aportación de este tipo porque estaban prohibidas por la ley

por tanto el presupuesto vasco del año dos mil doce se liquida sin ninguna aportación a las epsv de las entidades de previsión social de euskadi

se prorroga el presupuesto liquidado por tanto no hay ninguna aportación si el año dos mil catorce incorporamos al capítulo primero alguna previsión para hacer esas aportaciones

la situación presupuestaria de las diputaciones de los ayuntamientos no tiene por qué ser la misma ni mucho menos cada una tiene su propia circunstancia algunas

puesto que la dotación existía no hubo incremento de la masa salarial esto fue la mayoría

primero dotaciones de sobra suficientes para financiar efectivos que no estaban realmente ocupados y aprovecharon esos recursos

pero no era el caso del gobierno el gobierno vasco tiene las plantillas ajustadas y no tiene en el capítulo primero excedentes que le permitan financiar esas aportaciones por tanto financiar esas aportaciones supone inevitablemente

las leyes de presupuestos generales del estado aprobadas todo el mundo sabe con la mayoría absoluta del partido popular

estas son las condiciones estos son los términos en los que se mueve el gobierno vasco términos presupuestarios

de autorización de hacer aportaciones de las leyes de presupuestos

el gobierno vasco no lo puede hacer sin saltarse esa norma básica usted me dice y si no hubiera norma básica bueno si no hubiera norma básica ya se vería cuál es la situación pero no equipare las aportaciones a epsv

porque es completamente distinta yo ya sé que es completamente distinta sí en el caso

solamente se subordina al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que no es poco que no es poco objetivos de estabilidad presupuestaria que están impuestos

pero en el caso de las aportaciones a epsv la prohibición sigue patente repase artículo diecinueve apartado tercero de la ley de presupuestos generales del estado para el dos mil dieciséis no me obligue

que está aprobada por ustedes por el partido popular la normativa está ahí la prohibición es taxativa contundente no me obligue a que a someterme a los recursos de la abogacía del estado que sigue vigilando

y sigue vigilando la actuación de las administraciones públicas para asegurar que no se produce la más mínima desviación eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

señor consejero hace unos meses el dieciocho de junio se aprobó en este parlamento la ley de vivienda

se hace realidad el derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna se exige al gobierno vasco que el ochenta por ciento del dinero público en materia de vivienda se destine a la vivienda pública en alquiler esto durante los primeros cinco años y luego ya pasaríamos al cien por ciento se pretende que los más desfavorecidos es decir aquellas personas aquellos ciudadanos vascos en riesgo de exclusión social no se queden en la calle por no poder pagar su hipoteca nos encontramos por lo tanto ante una ley avanzada

que fue duramente criticada por el gobierno vasco y por el partido nacionalista vasco antes de su aprobación definitiva miembros del gobierno vasco

miedo a la sociedad dijeron que esta ley tendría un efecto mundial dijeron que esta ley provocaría un efecto presupuestario insoportable para las arcas públicas y dijeron que su aprobación obligaría

recortes sociales además el gobierno vasco y en concreto el señor erkoreka manipuló todo lo que pudo el contenido real de la ley

y oponerse a ella pero lo peor en este caso no es criticar la ley oponerse a ella o ni siquiera la insensibilidad social que este gobierno mostró en la tramitación debate y aprobación de la ley de vivienda lo peor son las mentiras las falsedades y tratar de transmitir miedo

el gobierno vasco por eso yo le pregunto señor consejero si mantiene el gobierno vasco que la aplicación de la ley de vivienda provocará un efecto presupuestario
insoportable que exigirá la aplicación de recortes sociales tal como en su momento el señor erkoreka nos dijo a todos eskerrik asko maneiro jauna

la debilidad económico financiera que incide en la formación de la oferta pública en alquiler y que actualmente tanto

sino de manera directa a través de un presupuesto público que tiene unos límites determinados eskerrik asko toña jauna maneiro jauna

sí vamos a ver señor consejero el señor erkoreka dijo que la aprobación de esta ley tendría un efecto llamada mundial se está produciendo este efecto llamada mundial o no se está produciendo este efecto llamada mundial fue una manipulación del erkoreka una simple mentira más habló el señor erkoreka y dijo que esta ley tendría un efecto presupuestario insoportable para las arcas públicas está teniendo ya un efecto insoportable para las arcas públicas o era otra manipulación habitual del señor portavoz del gobierno vasco y del propio gobierno vasco

esta ley o era también una falsedad del señor erkoreka y del propio gobierno vasco mantienen todo esto que ustedes dijeron o todo era una inmensa mentira

no vemos nada de esto no vemos ni el efecto llamada mundial ni vemos que la aplicación de esta ley tenga un efecto presupuestario insoportable que es lo que se dijo el incremento

en dos millónes de euros ustedes hablaron de un incremento adicional respecto a lo que ya teníamos de casi ochenta millónes de euros anuales y se ha demostrado que era falso y aunque fuera ochenta millónes de euros nosotros consideramos que lo mismo que la educación cuesta dinero lo mismo que la sanidad cuesta dinero

tener coste económico para las arcas públicas pero se trata en todo caso de una política

mantienen todo esto que ustedes dijeron efecto llamada mundial

en fin necesidad de aplicar recortes lo mantienen

no entraré en sus afirmaciones y contestaré a la pregu nta que usted ha hecho

que la inversión para hacer frente a las nuevas obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la ley de vivienda

que era el presupuesto destinado a las políticas de alquiler ascendía a más de sesenta y dos millónes de euros y que a esta cifra hay que añadir

más los ochenta y dos coma dos millónes de euros destinados a abonar los gastos de alquiler

por tanto dentro de las posibilidades presupuestarias existentes el ochenta y cuatro por ciento del presupuesto presentado para el dos mil dieciséis solo en el área de vivienda excluidas las partidas destinadas a fomentar la rehabilitación urbana tal y como dice la ley estará dirigido a ampliar el parque público para dar satisfacción al derecho subjetivo de vivienda beraz aurrekontuen posibilitateak aztertuz aurkeztutako

presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios lehendakari

hace una semana exactamente el pasado seis de noviembre el viernes pasado el lehendakari

se reunió con el señor gonzález el diputado general de álava y según se hicieron eco los medios de comunicación parece ser que las cuestiones

tuvieron el protagonismo esencial según el propio diputado general que

el lehendakari hizo suyos los planteamientos

le trasladaba y en ese sentido yo creo que es bueno que nos cuente el propio lehendakari qué va a hacer cuáles son los

más importantes que califica de esa reunión en relación con precisamente ese desarrollo logístico con foronda con las conexiones logísticas de álava después de esa reunión y de

tenemos planteado una interpelación a la señora oregi para entrar más a fondo en las cuestiones que tienen que ver con ese desarrollo logístico y con foronda

de la reunión y la intervención del señor gonzález hablaron

urkullu coincide con gonzález en apostar por álava como territorio logístico y urkullu apoya a gonzález para lograr pasajeros para foronda

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señor barrio efectivamente

ramiro gonzález en relación al desarrollo logístico de araba por su pregunta entiendo que el partido popular ahora pretende dar importancia

a la logística en general y el gobierno vasco y la diputación foral de araba ambos liderados por el partido nacionalista vasco

y apostamos por mantener la capacidad del aeropuerto de foronda defendemos ambas instituciones recuperar el puesto de inspección fronteriza y garantizar su actividad las veinticuatro horas del día tras el cierre decretado por el gobierno del partido popular esta es

en el comité de coordinación aeroportuaria y por otra parte en cuanto al corredor ferroviario compartimos tres objetivos culminar la llegada del tren de alta velocidad impulsar la terminal de jundiz

y ampliar la capacidad de arasur como puerto seco el gobierno vasco por lo tanto señor barrio está comprometido con la modernización de araba y apoya su capacidad industrial y exportadora y además

en el grupo de trabajo de la unión europea del corredor ferroviario atlántico eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

que trataron y que pretenden abordar sí que me gustaría un poco más de detalle porque efectivamente si urkullu

foronda tenga más pasajeros me gustaría saber cómo hay una posible solución que

con los alcaldes y los ayuntamientos del txorierri yo creo que puede ser una buena opción en ese sentido para traer vuelos se han pedido en loiu ampliación de horarios parece que hay muchas dificultades porque los ayuntamientos de la zona

a los vuelos de pasajeros que precisamente pueden venir perfectamente a foronda yo creo que es una buena oportunidad en este momento la pelota

en sus posibilidades de hacer para traer pasajeros

de foronda estamos viendo como el aeropuerto de foronda esta misma semana

competición estrecha del de foronda en relación con la carga o sea que eso está yendo bien está yendo bien en los últimos meses está yendo bien

está en el tejado del propio gobierno vasco en su tejado en esa capacidad de entender que el aeropuerto de loiu como el fuenterrabía como el de foronda pueden tener un concierto ser un por decir así un único aeropuerto y en ese sentido

con tres terminales en ese sentido pues ver que ahora que hay dificultades

no solamente de ampliación de horarios sino de ampliación incluso de sus

tener desde luego ese reflejo aquí nosotros nos gustaría verlo así nosotros entendemos que ha habido malas noticias

industrial de viap en el aeropuerto de foronda fue una mala noticia fue una incorrecta decisión pero en cualquier caso ahora la pelota está en su tejado para traer esos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio de cuántas cosas me ha hablado usted en un totum revolutum qué tiene que ver el polígono industrial con los pasajeros del aeropuerto de foronda

señor barrio me ha hecho la pregunta en cuanto a lo que fueron los compromisos de conexiones logísticas

y en todo caso ya que usted se refiere a foronda como representantes del partido popular y por lo tanto partido que gobierno en españa

durante cuatro años se han dado las condiciones idóneas para haber defendido los intereses de álava desde todas las instituciones y particularmente las gobernadas por el partido popular señor barrio

del aeropuerto de foronda es el gobierno de españa el titular del aeropuerto de foronda y también de la red ferroviaria y sin embargo en foronda se han dado pasos para atrás

y este ha sido el fruto del gobierno del partido popular eso sí hemos visto como en paralelo

en relación a zaragoza por las circunstancias que usted sabe que se dan en la mayor capacidad de una empresa ubicada en lo qué es de foronda hombre no me venga usted a plantear y a reivindicar lo del aeropuerto

liderado por el partido nacionalista vasco y lo ha escuchado a la consejera de medio ambiente y política territorial si alguien está defendiendo la complementariedad de los aeropuertos y por lo tanto también la promoción del aeropuerto de foronda es el partido nacionalista vasco tanto en lo que es aeropuerto de carga como también aeropuerto para vuelos transoceánicos o aeropuertos para vuelos también comerciales yo reafirmo el compromiso del gobierno con las plataformas logísticas

tanto desde ura como en infraestructuras de comunicaciones para mejorar la competitividad de foronda no solamente la competitividad está basada en lo que pueda ser la capacidad de atracción de vuelos

de las infraestructuras y le puedo asegurar que el gobierno vasco y diputación foral estamos trabajando de la mano en materia logística y de transportes porque nuestro único compromiso es defender los intereses de álava y euskadi por encima de cualquier otro

se suscribió un acuerdo de intenciones con la propiedad como usted bien decía

haciendo muy difícil y muy complicada por la gran cantidad de proveedores y acreedores

en más de un país es decir tenemos aquí las plantas de vitoria hay plantas en navarra hay plantas en el resto del estado hay plantas en francia y es muy difícil

dos mil quince se llegó a un acuerdo definitivo que las entidades financieras tenían que firmar

esta operación a fecha de hoy este acuerdo que afectaba a la deuda sénior la de los bancos

este proceso parece a día de hoy pero son noticias en este momento no oficiales pero el conocimiento que tiene el gobierno es que los bancos ya han acabado de firmar por tanto en este momento se encuentra en defensa de la competencia que tiene que firmar que no existe ningún problema y además se tiene que dar una homologación judicial

pero sin embargo las noticias que tenemos son que a pesar de que el grupo está sometido a tutela judicial y tenemos información solo como acreedores

entendemos además la situación compleja en la que están viviendo los trabajadores sin conocer

insisto sin ninguna fuente oficial es que estamos pendientes únicamente del proceso en competencia y del de homologación y que

todo el proceso finalizado y resuelto eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

en relación a la pregunta concreta sobre la empresa urbanext la negativa de lampar a entrar a participar aquí se ha comunicado desde el principio lampar por cierto gestionada no solamente por capital riesgo del gobierno vasco sino por una sociedad de reconocido prestigio y que ha trabajado mucho tiempo en este tipo de proyectos a partir de ahí

es cierto quedando únicamente pendientes decisiones relativas a sociedades de garantía reciproca

viable el proyecto desde el punto de vista financiero y las sociedades de garantía reciproca han mostrado su negativa sin embargo sí existe una financiación alternativa el programa gauzatu sigue teniendo la evaluación positiva hemos hecho un esfuerzo

lo que me gustaría señalar también es que no encontramos desde luego desde ningún punto de vista adecuado y usted no lo ha dejado ver del todo que los trabajadores con uno coma dos millónes de euros tengan el veinte por ciento del capital y alguien que viene de francia

se haga con el ochenta por ciento del capital cuando menos me reconocerá que no es una práctica muy adecuada eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

esa posibilidad la situación de candy al hilo de la actuación de su gobierno sería muchísimo más clara a día de hoy

porque gracias a la pasividad de su gobierno tuvieron que intervenir otras instituciones y como le decía lo habrán hecho bien mal o regular pero han mantenido la expectativa de que puede haber aquí una solución

la empresa o los trabajadores eso puede ser discutible nos puede gustar más o menos pero ahí son los trabajadores los que están tomando las decisiones y los trabajadores lo habían aceptado y además eso entra dentro de lo exigible legalmente para ser apoyados por el fondo lampar por lo tanto ni a su gobierno ni a mí

decirles a los trabajadores si eso es justo o injusto cuando ellos lo han aceptado y cumplen las obligaciones legales

los problemas de la cuestión de la viabilidad financiera han tenido varias reuniones con ellos han alimentado

de que esto no iba adelante a través del periódico a través de filtraciones de su departamento

de la respuesta que me iba a dar hoy a través del periódico del mismo periódico eso no es serio

cuestiones sobre la viabilidad del proyecto a mí no me corresponde tampoco decir si es viable o no no tengo el estudio de viabilidad

puede haber dudas en torno a ello pero lo que desde luego no hay ninguna duda

ni en la forma oportuna estas vías sobre la viabilidad todas las empresas tienen riesgos bueno todas no uno puede poner autopista radiales cuando quiebra le rescatan o puede hacer bancos perder todo el dinero que quiera ya le rescatarán es el capitalismo

en el que las pérdidas siempre se socializan pero el mundo de la pyme efectivamente está empresa puede tener riesgos pero creo que también

la garantía a día de hoy los trabajadores siguen apoyando este proceso los trabajadores ven esta posibilidad

esperan y exigen que el gobierno vasco cumpla con su responsabilidad y siga implicándose como en los últimos meses no en el inicio de este proceso lo hizo eta amaituko dut hain zuzen ere

nadie nos ha comunicado que el proyecto no es viable el gobierno vasco nos ha comunicado de forma reiterada su apoyo al proyecto no entendemos qué ha pasado fuimos víctimas de una injusta deslocalización y estamos en una situación realmente dura se nos ha agotado la prestación de desempleo
aún estamos a tiempo pedimos al gobierno vasco que mantenga su palabra y entre todos creamos una alternativa eskerrik asko casanova jauna tapia andrea

hauxe diote zehatz mehatz artículo ochenta y seis punto uno las convocatorias de las sesiones

etcétera se redactarán en lengua castellana o en la lengua cooficial en la comunidad autónoma a la que pertenezca la entidad artículo ciento diez punto uno será aplicable a la redacción de las actas lo dispuesto en el artículo ochenta y seis punto uno en cuanto a la utilización de las lenguas

en y entre ellos y en su relación con los objetos privados con plena validez y efectos jurídicos

la utilización de una u otra lengua por cualquiera de los poderes públicos en ellos radicados tenga en principio la misma validez jurídica

el cuatro coma dos por ciento del pib de euskadi dos mil ochocientos millónes de euros un dato que rebela que la contribución de la lengua vasca a la economía del país vasco es más que considerable

y respecto a otros sectores se sitúa por detrás de sanidad ocho coma ocho por ciento turismo cinco coma ocho por ciento educación cinco coma cinco por ciento

que tiene un dos coma uno por ciento sailburuordeak aipatu

asimismo se ha remitido el estudio completo al parlamento vasco y próximamente se dará cuenta detallada de todos los por menores del mismo mediante comparecencia parlamentaria en comisión

en consecuencia ante la pregunta de si valoramos positivamente que existen espacios autogestionados y participativos he de responder que por supuesto que sí

como no podía ser de otra manera por supuesto que usted está de acuerdo con los espacios participativos a nivel cultural pero como siempre lo hacen de boquilla

ustedes priorizan la inversión cultural en el continente es decir en los edificios más que en el contenido en la creación cultural y en la cultura de base

antes que la cultura social emanada del pueblo y mientras tanto envuelven en celofán su pseudo plan de kultura auzolanean

priorizan la propiedad privada y los intereses privados al interés común priorizan y ponen por delante los intereses de las constructoras y temen mucho muchísimo la actividad cultural generada de manera autogestionada

ustedes no quieren jóvenes que no dependan de las instituciones para organizarse

los quieren dentro de su modelo de consumo cultural ustedes podrán defender el dinero y los intereses privados y privativos creando nuevos solares como ya lo hicieron con kukutza pero la realidad es que siempre tendrán en frente de sus excavadoras a gente dispuesta a crear alternativas en sus calles en sus barrios en sus ciudades

kortxoenea bizirik nahi dugula y tenga usted una cosa clara al igual que el gobierno que aquí tampoco nadie se rinde

en todo caso insisto este aspecto poco tiene que ver con la opinión del gobierno vasco con respecto a la existencia de espacios culturales autogestionados este gobierno apuesta por la creación cultural en sus diversas modalidades

por la colaboración público privada por la gobernanza compartida y por la gestión de espacios por parte de los jóvenes todo ello en beneficio de una cultura más accesible para la ciudadanía
que es y debe ser nuestro objetivo principal y trabajamos en ello eskerrik asko